se ha repartido un documento con la ordenación de las votaciones

y en ese documento en las propuestas de los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos falta la resolución número dos que será la primera que votaremos por lo tanto incluyan

en el listado en el apartado de las propuestas de los grupos nacionalistas

se empieza por la tres cuatro cinco seis y siete es una de las votaciones bueno pues antes de esa votaremos la dos que faltaba había saltado de listado

a proceder a votar según lo establecido en el documento que les hemos repartido la primera votación es la propuesta transada número tres y cuatro de bildu con la uno de elkarrekin podemos izquierda unida pueden votar con el reloj o sea ahora lo pondrán en marcha

por lo tanto queda rechazada procedemos a la votación de las propuestas del grupo mixto

dos cuatro cinco siete ocho y nueve

las propuestas mencionadas siguiente votación la resolución tres y seis de euskal herria bildu elkarekin podemos perdón del grupo mixto

rechazadas siguiente votación la propuesta número dos de elkarrekin podemos

quedan rechazadas siguiente votación las resoluciones cuatro y nueve de elkarrekin podemos

por lo tanto queda rechazada siguiente votación las resoluciones tres y ocho de elkarrekin podemos

siguiente votación las resoluciones de elkarrekin podemos doce dieciséis veinticinco veintiséis treinta treinta y uno treinta y dos treinta y cinco treinta y seis treinta y nueve cincuenta y ocho y sesenta y cuatro

siguiente votación resolución de elkarrekin podemos número diecisiete

quedan rechazadas siguiente votación las resoluciones de elkarrekin podemos

cinco hamaika ah la anterior

veintiocho treinta y cuatro cuarenta y uno cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta y tres y sesenta y uno

procedemos a las siguientes resoluciones de elkarrekin podemos cinco once catorce

cincuenta cincuenta y cinco cincuenta y seis sesenta sesenta y dos y sesenta y tres

quedan rechazadas siguiente votación de elkarrekin podemos las resoluciones dieciocho veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veintinueve treinta y ocho cuarenta cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y siete cincuenta y cuatro cincuenta y siete cincuenta y nueve sesenta y cinco y sesenta y seis

votación propuestas de resolución de eh bildu

dos seis siete ocho diez once y doce

votación de euskal herria bildu nueve y trece

rechazadas propuestas del grupo popular vasco ciudadanos votación de las resoluciones

quedan rechazadas votamos la resolución número dos del grupo popular ciudadanos

aprobada la resolución número dos procedemos a la votación de la resolución

procedemos a la votación de las resoluciones del grupo popular ciudadanos números seis y ocho

rechazadas pasamos a la votación de las resoluciones de los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos votamos la resolución número dos

queda aprobada procedemos a la votación de las resoluciones tres cuatro cinco seis y siete del grupo nacionalistas vascos y socialistas vascos

quedan aprobadas siguiente votación del mismo grupo los mismos grupos uno ocho nueve diez once y doce

quedan aprobadas votación de la resolución número trece grupo nacionalistas y socialistas vascos

queda aprobada siguiente votación la resolución número catorce de nacionalistas y socialistas vascos

resolución de socialistas y nacionalistas vascos número dieciséis

siguiente resolución de los mismos grupos nacionalistas y socialistas vascos número diecisiete

queda aprobada siguiente votación resolución dieciocho

siguiente votación resoluciones diecinueve veinte y veintiuno

quedan aprobadas y salvo error u omisión última votación la resolución número veintidós del grupo nacionalistas vascos y socialistas vascos

queda aprobada habiendo terminado las votaciones se